señor consejero no me ha contestado a lo que le he preguntado le he dicho

del servicio de teleasistencia que se recoge en el decreto y en la cartera de servicios está claro cuál ha sido la voluntad del legislador

está claro una voluntad acordada para nada

en la definición la dualidad a la que usted hace referencia para nada se cita

le repito la definición servicio

de apoyo e intervención social enmarcado en el contexto de los servicios sociales de atención primaria que permite a las personas usuarias a través de la línea telefónica y con un equipo de comunicación e información específico

permanente las veinticuatro horas del día todos los días del año atendido por personas específicamente preparadas para dar respuesta adecuada

o de emergencia ese es la definición del servicio de tele asistencia y si realmente queremos hacer otro tipo de servicio

fijemos los objetivos pero hoy lo que está recogido en el decreto y en la cartera de servicios nada tiene que ver con eso nada tiene que ver con eso y tampoco me ha contestado a qué entiende usted por potencial ilimitado

qué quiere decir osatek cuando habla de potencial ilimitado yo antes

de españa tiene una actitud recentralizadora

oportuno recentralizar en torno al servicio de teleasistencia de ser

que las personas que estén dentro de este servicio puedan demandar

por el artículo treinta y tres saltándose la ley saltándose el decreto saltándose la cartera de servicios prestar aquellos ilimitados que puedan necesitar los usuarios del servicio de teleasistencia yo creo señor consejero que la teleasistencia está plenamente definida y por lo tanto las actuaciones que se deriven en ese servicio se tendrán que recoger en la definición y si no tendremos que cambiar el decreto

y tendremos que cambiar los medios porque la deriva que está tomando es

sospechosa muy sospechosa ustedes ponen equipos técnicos de lo que se les ocurre sin concursos públicos

descarada descarada haciendo servicios que no están recogidos que no están recogidos en la definición y la deriva es

por lo tanto señor consejero yo les pido que el servicio se acoja a la definición que está recogido en el decreto y en la cartera de servicios
para qué tenemos ley para qué tenemos decreto para qué tenemos cartera de servicios eskerrik asko lópez de ocariz andrea toña jauna zurea da hitza

en general el apoyo personalizado a procesos administrativos de relación con el sistema socio sanitario supone una oportunidad para facilitar a la población de betion la relación con los servicios públicos y una mejora

de la demanda me pregunta

lópez de ocariz si el servicio técnico de atención social

cuál es la definición cuál es

bien se ha dado cuenta en esta cámara de la calidad del servicio y del grado de satisfacción de los usuarios ellos están contentos ellas están contentas pero en esta ocasión quisiera además trasladarle los retos

para el periodo dos mil quince y dos mil dieciséis y que son una continuación del denominado plan betion avanza y evoluciona y las áreas estratégicas son implantación de la teleasistencia en las zonas rurales

alcanzar colectivos de discapacidad y salud mental que necesitan atención sanitaria seguridad en el hogar seguir con la implementación de la teleasistencia avanzada mediante

apoyos a las personas cuidadoras hasta aquí la exposición de motivos por los que considero que el servicio público de teleasistencia dependiente

se ofrece no solo en condiciones adecuadas sino que dispone de calidad contrastada

a nivel internacional en la atención domiciliaria centrada en la persona y que es pionero en el estado en su dimensión socio sanitaria cierto vale su innovación en la aplicación de la coordinación socio sanitaria como pilar articulador de la prestación del servicio es la clave del éxito y lo más importante atiende debidamente a personar usuarias más de treinta y cinco mil

suponen nada menos que un ocho por ciento de cobertura de los mayores de sesenta y cinco años

proveedores únicos del servicios socio sanitario termino a veces no se cumple la ley por debajo

a veces puedo decir con un exceso de dotar al ciudadano de más servicios cumplimos la ley la llenamos y la completamos incluso con lo que literalmente no está escrito en la ley si usted cree que somos sospechosos de algo

pero no me diga que no cumplimos con la ley cumplimos con eso y con más y no tenemos ninguna intención descarada ni sospechosa de hacer algo que beneficie

personas que necesiten estos servicios eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamabigarren

intentaremos responder brevemente a esta pregunta que no es una pregunta retórica sino que es una pregunta que esta sociedad se tiene que formular qué ha pasado con euskaltel seré breve lógicamente y trataré de ir rápido porque es una cuestión bastante densa en agosto por empezar por algún punto en agosto del dos mil doce esta cámara

en agosto en pleno agosto para autorizar con el voto en contra eso sí de ea y aralar

la venta de la red de fibra óptica o de parte de esa red y de las acciones de euskaltel propiedad del gobierno vasco a compradores interesados en los mismos

así como de las acciones en poder del grupo mondragón y endesa y de parte del paquete en poder

dos fondos internacionales de inversión se hacían con el cuarenta y ocho por ciento de euskaltel investindustrial y el estadounidense trilantic por cierto

la titularidad de las acciones estos fondos colocan a su equipo en el consejo de administración de euskaltel y comienza la locura neoliberal los postulados más agresivos del capitalismo comienzan a aplicarse de la forma más extrema

estos fondos tenían clarísimos cuáles eran los objetivos de su operación entrar en euskaltel adaptarla a los gustos del mercado sacar la bolsa y embolsarse la mayor plusvalía para ello era clave

que tuviera la menor plantilla posible y que tuviera un equipo directivo plenamente comprometido con esta labor

de estimulo para comprar sus voluntades ha existido desde la privatización de euskaltel una estrategia premeditada entre otras cuestiones para la destrucción del empleo

pero es así se ha destruido empleo de forma premeditada no porque hubiera pérdidas o porque el funcionamiento de la empresa lo hiciera imprescindible sino porque los gestores de la misma querían adelgazar la plantilla para engordar el precio de salida a bolsa y embolsarse los sustanciosos bonus que quizás deberíamos llamar botín

aligeradas de esa molesta carga que se llaman o que ellos llaman trabajadores

de jubilaciones anticipadas de no reposición de jubilaciones y de externalización de servicios

eta kaskarragoetan jarraitzen dute bere lana garatzen euskaltel era una empresa rentable mientras esto estaba sucediendo incluso en el periodo de crisis entre el dos mil ocho y dos mil catorce

el coste de la plantilla incluso cuando era de quinientos cincuenta personas era de tan solo treinta y cuatro millónes

ni siquiera la rentabilidad de la plantilla o de la empresa por una plantilla sobredimensionada

del que quedaba es significativo además la congelación salarial de la plantilla mientras se subían los salarios de la alta dirección pero esas externalizaciones además que no son una destrucción pura de empleo pero sí

pérdida de calidad en ese empleo externalizado afectan además a partes sustanciales de lo que es una empresa tecnológica ez dira kanporatu ez dira esternalizatu

aquellas de mayor requerimiento tecnológico no estamos hablando del catering o de la limpieza la transferencia del sistema informático los sistemas informáticos del motor tecnológico de la empresa a gfi con la salida de treinta y cinco trabajadores y la de operaciones y mantenimientos a zte con la salida de ciento cuarenta y cinco trabajadores han dejado a euskaltel convertida en una empresa

es decir todo el núcleo tecnológico de la empresa prácticamente en su totalidad ha sido externalizado

de servicios en el cual el componente tecnológico esta fuera incluso habiendo producido una transferencia de tecnología y de know how a estas nuevas multinacionales

capital tecnológico por eso podemos decir que en euskaltel estamos ante lo que se podría denominar como un proceso de descapitalización tecnológica dirigido paradojas de la vida por la persona que ostenta el puesto de presidente de innobasque la agencia vasca de innovación

y a la red de distribución y tiendas para ajustar los márgenes provocando serios problemas de viabilidad tal y como hoy mismo hemos visto denunciado en la prensa igualmente y siempre en áreas de la rentabilidad cortoplacista se han sustituido empresas del país por contratas extranjeras

los fondos de inversión compraron sesenta millónes de acciones a tres euros y ahora los van a vender a doce la plusvalía de esta operación es de quinientos cuarenta millónes a los que hay que añadir el dividendo extraordinario del que luego hablaremos

percibidos durante estos dos años calculamos que los beneficios netos obtenidos en dos años por los fondos trilantic e investindustrial superan los seiscientos cincuenta millónes de euros

en dos años en una estimación prudente porque puede ser algo más estos fondos no han sido socios industriales no han aportado nada ni producto ni tecnología ni mercados

solo capital e imposiciones como la simbólica pero dolorosa disolución del equipo ciclista la única aportación tecnológica de los fondos integrados en internacional cable

ha denominado tecnología de incentivación del equipo directivo

creo que aquí se ha jugado sobre seguro que había información y que había un plan que se sabía que el valor real de la empresa era mucho mayor que el que se estableció

que se han aprovechado de la necesidad de la incompetencia o de la complicidad de quienes malvendieron sus acciones en el peor momento que en el mundo de la bolsa hay listos y tontos y que en este episodio algunos han hecho el papel del pueblerino recién llegado a la ciudad al que le dan el timo de la estampita

los bonus no voy a hablar mucho de ellos porque afortunadamente era una cuestión que queríamos hoy denunciar pero afortunadamente esta cuestión

el reproche social que se merece es un tema ya conocido y no me voy a extender más que para mostrar la repugnancia que producen estas actitudes

este dinero de los bonus o del botín está manchado con el sufrimiento de los despedidos de los subcontratados de los precarizados es un dinero sucio es el pago a una traición

pero es igual de inmoral y cuantitativamente supone un lastre muchísimo mayor para la empresa se piden créditos para repartir dividendos doscientos millónes para repartirse cien para kutxabank y cien para los fondos

no para invertir no para investigar no para desarrollar productos nuevos no para crear un centro de investigación no para mejorar el país no

para repartirse el botín quien negocia leoninamente las condiciones laborales de sus empleados no tiene reparo en endeudarse en doscientos millónes para repartírselos

a lo que han hecho y a quienes lo han hecho propongo que euskaltel utilice como lema para su próxima campaña publicitaria el grito de guerra de la bruja avería

esan duzunean destrucción de empleo bueno destrucción de empleo no lo que ha habido es una externalización goazen harira

de telecomunicaciones son una base fundamental del entramado empresarial de cualquier país y más en este que a pesar de ser pequeño una tecnología importantísima a pesar de ese tamaño y que cuenta en estos momentos con unos niveles de infraestructuras y de servicios tecnológicos avanzados que nos permiten ubicarnos

a la vanguardia de los países europeos y comparable con los mejores y por cierto euskaltel es una empresa de servicios de servicios avanzados diferentes como le he comentado en euskera servicios avanzados que hay que continuar trabajando al servicio de la industria de este país por supuesto

compite con operadores líderes mundiales y es como tal además líder en el sector de las telecomunicaciones de euskadi una empresa estratégica para el país y no lo podemos olvidar dando servicios de banda ancha ultrarrápida televisión entre los primeros telefonía fija telefonía móvil

en todo lo que es el segmento que trabaja en este sector euskadi decíamos además como tal es una comunidad que se encuentra desde luego la primera del estado y comparable con las mejores de europa y para hacer todo esto sí es cierto que lo público hizo un esfuerzo importante este proyecto se lanza desde lo público viendo que era un proyecto estratégico

o fue la propia acb donde lo público arranca le da el impulso necesario

y una vez que es viable que la iniciativa privada toma el lugar de lo público como debe ser la iniciativa pública se retira que es lo que debe hacer para tomar posición en otras empresas lo hizo en itp lo hizo en acb lo hizo evidente porque desde luego lo público no tiene vocación de ser propietaria de una empresa sino de lanzar empresas que son estratégicas para el país y esta lo fue y se hizo igual que en cualquier otro caso en un entorno en el que los cambios tecnológicos y la competencia empresarial son

para poder continuar trabajando es clave esa iniciativa pública inicial pero desde luego una vez que la empresa evoluciona es clave también la retirada de lo público

de la compañía de los accionistas públicos en diciembre de dos mil doce se incorpora como usted dice un par de fondos de inversión

al accionariado de esa empresa y todos sabemos cuándo se incorpora un fondo de inversión cuáles son las reglas de actuación de una empresa cuáles son las reglas de actuación porque esos fondos de inversión vienen a capitalizar la empresa sí cuando es necesario porque la capitalización dos mil doce dos mil quince ha sido importante para esa empresa y estrictamente necesaria

no son hermanitas de la caridad por tanto vienen a ganar dinero y hacer que la empresa sea viable y así lo es en esa fecha no obstante kutxabank y el nuevo socio acordaron una cosa muy importante para euskadi mantener el arraigo de euskaltel en euskadi y firmaron un acuerdo

a mantener a preservar el domicilio social fiscal y la sede de esta empresa en euskadi a mantener la marca los activos fundamentales me refiero activos de inversión y personas también para desarrollar la actividad desde euskadi y eso no es desdeñable es la entrada de unos fondos de inversión con sus necesidades pero

de los locales para que eso siga manteniéndose aquí hoy euskaltel se enfrenta a la salida a bolsa y una salida a bolsa representa para cualquier empresa una serie de ventajas competitivas en este caso la propia compañía va a reforzar su posición como operador líder

y el futuro desarrollo le va a dotar de medios que a día de hoy no tiene le va a dotar de notoriedad en mercados internacionales le va a permitir

y desde luego va a permitir que esta empresa sea competitiva a futuro a la vez en el desarrollo del proceso de análisis de esta venta

que es el mantenimiento de esos compromisos de anclaje al territorio que fueron acordados previamente

su intención de mantenerse como socio de referencia en euskadi por tanto como gobierno no podemos más que añadir que nos encontramos ante una decisión tomada

el gobierno no interviene en estas decisiones de empresas privadas puesto que son legítimas evidentemente nuestra tarea es la de generar un marco que sirva para que empresas como esta vengan a euskadi y se mantengan aquí ese es el objetivo generar riqueza y continuar con el desarrollo de una empresa como esta ese es el objetivo primordial y desde luego lo que no podemos olvidar es que la salida a bolsa de una empresa es bueno en sí mismo per se para un país y desde luego no podemos criminalizar eso cuando una bolsa

varias cosas una que es exitosa en su sector dos que es competitiva tres que ha desarrollado un tamaño suficiente como para poder llegar a esa salida a bolsa y por supuesto que tiene expectativas de futuro porque la bolsa mide expectativas de futuro tiene unas expectativas suficientes como para ser atractivo para otros inversores

crecer y tener dimensión como para tener empresas en bolsa porque eso no significa nada más que que somos competitivos finalmente me voy a referir al tema de los incentivos a los que usted también ha hecho referencia a pesar de que es pública y publicada la opinión de este gobierno

y somos conscientes a la vez que las empresas que son de capital privado como la mayoría y algunas en las que existen fondos de inversión

diferentes como las que hemos visto aquí habituales para altos cargos y directivos

pero no es el modelo de empresa que pretendemos desde luego impulsar desde el gobierno sobre todo si la finalidad

es la de una capitalización personal de los beneficios de estas empresas ese no es el modelo no obstante en el caso de euskaltel además del éxito profesional

de la estrategia que han llevado sus accionistas y su equipo directivo ubicarse en estos momentos ahí del arraigo que han conseguido mantener en euskadi han manifestado hasta este momento su compromiso y su responsabilidad para con este país y aunque hemos alertado de lo que podría suponer el proceder de accionistas que legítimamente

hábitos con los que no estamos de acuerdo estoy convencida no me consta que a día de hoy los directivos y altos cargos de euskaltel van a responder positivamente a ese compromiso de empresa vasca a ese compromiso con el arraigo en euskadi con el mantenimiento con un compromiso social y que van a volcar

en inversión en la propia empresa para hacerla crecer para mantenerla arraigada aquí y para conseguir que los trabajadores y trabajadoras empezando por el equipo directivo y terminando por el último trabajador

no solo de las decisiones sino además del capital de la empresa un modelo que desde luego creemos que redunda en beneficio de este país eskerrik asko eskerrik asko

bueno dónde están los escándalos en euskaltel pues mire aquí además está usted en la foto

la sorprendida cuando le digo que está rodeado de escándalos me parece muy clarificadora su actitud yo le vengo

y usted la mayor parte de la intervención la ha dedicado a leerme el folleto que ha mandado a la comisión nacional de mercado de valores euskaltel haciendo promoción de los servicios que oferta y las cosillas de

lo que estamos cuestionando entre otras cosas es por qué como usted dice en este país hay una política en que lo que es rentable se privatiza y lo que es deficitario

el gobierno no está para tener dinero en empresas por qué no por qué no

y fue el anterior gobierno efectivamente pero con los votos favorables del grupo que sustenta al actual y precisamente en boca de quien hoy es consejero de economía aquí ha habido un pelotazo

porque la sociedad demanda que se aclaren cómo es posible que se multiplique el valor de una empresa por tres en dos años cuando no ha habido ningún tipo de inversión

estamos hablando de especulación pura y dura y estos fondos

absolutamente negativa para la plantilla y para el país esto no es una casualidad aquí ha habido una exigencia y cuando se invita a la cena

luego no se extrañen de que ustedes terminen o todos nosotros terminemos siendo la cena y además es que aquí no había sorpresa

y aplican unos protocolos de intervención en las empresas muy claros en los cuales la plantilla

en las páginas de bolsa de los periódicos cuando cualquier grupo comunica que va a despedir a no se cuántos miles de trabajadores

porque estamos la bolsa y los mercados en realidad son unos piratas que lo que quieren es ganar dinero desvinculándose por completo de la inversión productiva

que ustedes trajeron a euskaltel y estas son las consecuencias de andarcon este tipo compañías

porque cuanto antes hablamos de euskaltel hablábamos de arraigo de tecnología de cercanía de una buena imagen del equipo ciclista y ahora hablamos de lehman brothers

y ha cambiado el modelo y efectivamente nosotros creemos que hori salatu behar dela

creemos que una empresa una fundación que se dedica a la innovación tecnológica no puede tener como presidente a una persona que ha dado un espectáculo éticamente tan lamentable

y que además ha conducido a su propia empresa a una descapitalización tecnológica que va justamente en el sentido contrario

en este país aquí lo que necesitamos y lo que está pasando desde luego es un reflejo de cuál es la política industrial o la ausencia de política industrial y yo me alegro además

aquí parece que lo público solo está para asumir pérdidas está para lanzar empresas y para que luego el beneficio se lo embolsen cuatro particulares y además me dice el arraigo al país está garantizado es cierto que hay una serie de acuerdos que blindan una serie de cuestiones

el papel de garante de ciertas cuestiones que ha desarrollado kutxabank en euskaltel es para echarse a temblar

por kutxabank en el consejo de administración de euskaltel no están pensando en que lo que a ellos les gustaría y su modelo es hacer en kutxabank lo mismo que han hecho en euskaltel si con el cuarenta y nueve por ciento del accionariado que estaba en manos de kutxabank ha permitido todos estos desmanes cuando quede en manos del treinta por ciento o en propiedades únicamente

aquí puede pasar cualquier cosa eta uste dugu que aquí hay una responsabilidad hay una dejación de funciones por parte de su gobierno no sé si dolosa o culposa pero desde luego lo que está pasando en buena medida
se puede atribuir a su actitud eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

decía usted que ponemos dinero en empresas evidentemente el modelo que funciona en este país ha funcionado durante mucho tiempo

público privados por los cuales actúa para por una parte poner en marcha algunas empresas realmente tecnológicas como eran estas o donde realmente existen estrategias de país las pone en marcha las hace crecer ayuda a que funcionen y después evidentemente las vuelve

quedan en manos privadas porque ese dinero lo vuelve a utilizar el gobierno para poner en marcha otras actuaciones pero eso no solo ocurre con fondos de inversión ocurre con

actuando sobre empresas y el dinero que se va devolviendo se va utilizando para otras actuaciones y es la forma de seguir haciendo país porque si no

actuando como un gobierno que no está dejando actuar a la iniciativa privada que es la que realmente tiene que actuar en determinados momentos

usted me dice que la empresa se ha multiplicado por un número increíble no sé si entendemos que la salida a bolsa

existe expectativas y eso es lo que se está pagando pero desde luego

que el arraigo la tecnología y los servicios siguen estando como en estos momentos

qué está dando en qué se basa para decirme que no se están dando servicios tecnológicos desde euskaltel

como el mantenimiento por ejemplo en eso se está basando usted y el resto de personas que están en esa empresa la empresa como tal no la ponga en duda sigue funcionando perfectamente por tanto vamos a ir a las cosas a llamarlas cómo se deben llamar y la política industrial de este país se basa precisamente en eso

en ayudar en colaborar en hacer inversiones diferentes hoy con una empresa y mañana con dos y pasado con tres ese es el objetivo pero desde luego la permanencia en una gran empresa no es el objetivo del gobierno ayudar en los momentos difíciles sí y eso nos lo piden un día sí y otro también pero parece que hoy ya no o sea cuando la empresa está en dificultades entonces qué hacemos ayudamos o no en qué quedamos porque hoy me dice que sí mañana que no en qué condiciones

la hacemos que sea rentable y después nos vamos para seguir ayudando a otras y cuando son estratégicas la ponemos en marcha ayudamos a que crezca y después nos vamos a poner en marcha otra ese es

desarrollar la economía de su país y eso es lo que se está haciendo y eso es lo que se ha hecho con esta empresa y por favor en una empresa cien por ciento privada cien por ciento privada

el modelo de empresa de este país que de alguna forma soportar el gobierno quiere soportar el gobierno es un modelo de empresa transparente donde exista participación de los trabajadores

en el proceso productivo donde exista participación también en las ganancias que se produzcan en la empresa y donde exista participación por qué no en el capital de la empresa por qué para fomentar el arraigo para fomentar la implicación de las personas

y con ese objetivo hemos emplazado a los directivos de euskaltel en estos momentos para que todo ese bonus quede

y para que se dé esa implicación y ese arraigo en euskadi ese es el modelo que fomentamos y de acuerdo con eso actuamos nada más pero insisto empresa cien por ciento privada como la mayoría no casi el cien por ciento de las empresas de este país y eso es lo que pretendemos que este país crezca sobre cuantas más empresas mejor

de mayor dimensión competitivas internacionalizadas y tecnológicas

su modelo no es ese lo entiendo pero no lo comparto eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

gracias presidenta consejeros consejeras señorías buenos días

una semana el informe de fiscalización de la cuenta de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco para el ejercicio dos mil trece que realizó el tribunal vasco de cuentas públicas se trata de la fiscalización de la prórroga del ejercicio presupuestario dos mil trece que ejecutó el gobierno vasco al tener que retirar el lehendakari urkullu el proyecto de ley de presupuestos

debido a las enmiendas a la totalidad que presentamos algunos grupos entre ellos el grupo socialista en dicha fiscalización se establece en opinión del tribunal sobre el

que los créditos iníciales de pago del presupuesto prorrogado incluyen un importe consignado aproximado de ciento siete millónes de euros incumpliendo en régimen de prórroga presupuestaria regulado en el apartado b del artículo

de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario y es por ello señor consejero que le preguntamos qué acción o acciones tiene prevista realizar el gobierno vasco para que en el futuro una actuación como la que ha sido cuestionada por el tribunal

no sea o no vuelva a ser objeto de opinión de incumplimiento de legalidad por el tribunal vasco de cuentas públicas gracias eskerrik asko corcuera

gracias presidenta entiendo consejero entonces que no van a hacer nada porque consideran ajustado el tema y la intencionalidad

y lamento si no que no me haya respondido a la pregunta y que no me haya planteado ninguna medida a adoptar para evitar hechos como los que han ocasionado ese incumplimiento de la legalidad de una prórroga presupuestaria porque es cierto consejero que en las alegaciones que hace su departamento en ese informe se pone como excusa que esos créditos prorrogados suponían el uno por ciento del presupuesto por lo tanto obvian la ley porque la ley lo que prohíbe es la consignación en sí misma y

si su opinión consejero que entiendo por la respuesta que me ha dado es que sí y es el mismo tenor que las alegaciones presentadas yo entiendo que tendría que haber usted activado medidas para modificar la ley con el fin de no tener que hacer ninguna interpretación de lo que el tribunal

en su informe y que por eso hoy no nos a propuesto nada al respecto alega además su departamento en ese informe al menos así consta en ese informe que no habría habido necesidad de prorrogar los ciento siete millónes que critica el tribunal porque en su momento tuvieron que hacer retenciones de crédito por un importe cercano a los seiscientos millónes de euros para cumplir con el objetivo de estabilidad

de la rebaja de la disminución de ingresos y por lo tanto que el resto de créditos que se cuestionaban por parte del tribunal lo que corresponde en esa partida cuya naturaleza

y usted sabe consejero tan bien como yo que cuando el tribunal vasco de cuentas públicas mantiene en el informe definitivo de fiscalización su opinión sobre el incumplimiento de la legalidad

es porque habiendo sido conocedor de las alegaciones que hace su departamento no las ha considerado satisfactorias

que ustedes incumplieron las disposiciones legales en materia de régimen presupuestario y por lo tanto no se ajustan a la legalidad lo que se hizo y lo que más me preocupa y debiera preocuparle a usted es que no ha planteado ninguna medida para corregir esa situación porque la entienda ajustada a derecho y es lo que no casa su opinión sobre la legalidad con el informe de fiscalización del tribunal vasco de cuentas públicas

es nuestra intención remitir dichos proyectos de ley a consejo de gobierno en el presente ejercicio

abierta flexible y transparente que permite realizar un seguimiento de la planificación y de la actuación normativa del gobierno y por ello cada seis meses se realiza un documento de seguimiento que recoge los posibles cambios y las novedades del mismo beraz hor badago

y las complicaciones y contratiempos que se producen habitualmente en la tramitación de las normas sabe perfectamente que es prácticamente imposible vaticinar con exactitud

por ello el calendario legislativo debe servir como instrumento de información y orientación

presidenta señorías señor consejero señoras consejeras buenos días de nuevo

sirva también para hacer un análisis a través de este instrumento parlamentario de situación en relación con la donación y también

de cara a la temporada de verano conocemos bien cómo estamos en euskadi

conocemos desde la comisión de salud del parlamento el buen trabajo del centro vasco de transfusiones y tejidos

en las campañas de recogida de sangre anualmente como tiene que ser teníamos pendiente todavía una comparecencia

que supongo se realizará en septiembre donde veremos cómo ha ido el verano de cara a saber cómo va la campaña de cara a algunas informaciones

cómo afronta el verano en lo relativo a la donación de sangre después de algunas informaciones recientes después de constatar que en los últimos años además en euskadi

de españa también ha descendido algo el nivel de donaciones y eso es un hecho que lo ponen de manifiesto

y como decía antes según recientes informaciones que se refieren a las necesidades de donación de sangre para los meses de verano en euskadi se pone de manifiesto y leo

tejidos humanos donde desde hace años están centralizados los bancos de sangre de los tres territorios las donaciones han disminuido durante el último año y las reservas

el riesgo de resultar insuficientes también se decía que el periodo estival ha supuesto tradicionalmente un descenso de donaciones

más intenso por lo que decían las informaciones en agosto bajaron un cuarenta por ciento el año pasado durante ese mes en euskadi se contabilizaban cuatro mil cuatrocientos diez bolsas donadas

en total en junio julio y agosto del año pasado se realizaron diecisiete mil setecientos noventa y siete donaciones en el país vasco

lo que significa también decían esas informaciones que hubo

según responsables también y lo hemos visto en diferentes informaciones

y lo hemos hablado también con algunos de ellos de las asociaciones de donantes de sangre sería necesario para estar tranquilos unas mil trescientos bolsas más de sangre en estos meses de verano es una cifra

y nosotros la reflejamos en esta solicitud de información esas mismas informaciones constatan que las reservas se encuentran en este momento un veinte por ciento por debajo de lo habitual

es esa la situación que se describe o que hemos podido conocer en informaciones referidas

hay que tomar medidas o hay que valorarla por lo menos de cara a la solución a estimular en su caso la donación de sangre

también en verano por parte de los donantes habituales y a los que

de la cultura no solamente van a ser campañas lógicamente no solamente van a ser llamamientos puntuales tiene que ser una cuestión

mayor pero bueno vamos a ver un poco como afrontamos precisamente en ese riesgo de insuficiencia de reservas vamos a ver por ello el gobierno vasco nosotros entendemos como responsable de la recogida de sangre desde luego en la comunidad autónoma vasca debe de

en lo relativo al stock de bolsas de sangre para su uso ordinario y extraordinario en su caso

presente o las necesidades de comunidades autónomas en casos

que todos sabemos cómo funciona y que es un trabajo lógicamente sanitario médico y solidario también en cualquier caso todo lo que tiene que ver con la recogida de sangre en otras informaciones ya han hecho referencia alguna portada algún titular de algún periódico euskadi necesita sangre las reservas se encuentran un veinte por ciento por debajo de lo habitual

en esta época se utilizan más bolsas de hematíes que las que dan los ciudadanos también decía que los últimos años las donaciones están descendiendo entre un tres por ciento y un cuatro por ciento incluso a nivel

en estas claves y en este marco de actuación y ante estas noticias queremos preguntar y queremos saber del gobierno con qué criterios aborda el departamento de salud del gobierno vasco la recogida y almacenaje de sangre

retroceso de reservas en años anteriores y del riesgo de insuficiencia del stock

eguerdi on guztioi señor barrio en principio agradecerle

hablar de la donación de sangre y poder fomentarla

del centro vasco de transfusión y tejidos humanos desde finales de la década de los ochenta y con el que colaboran activamente

y no remunerada no siendo permitida la donación de sustitución dentro del círculo social y familiar de los pacientes como forma de obtener componentes sanguíneos de forma regular tal y como ha mencionado le voy a dar una serie de datos para hacernos una idea ajustada y veraz

de hemoderivados en euskadi el número total de donaciones de sangre en el dos mil catorce fue de noventa y uno mil trescientos donaciones lo que supuso una media de cuarenta y dos donaciones

habitantes año este año hasta el pasado treinta y uno de mayo

lo que supone un cuatro por ciento menos en misma fecha del año anterior que me parece que coincide con la cifra

la media anual de donaciones en el estado es de treinta y siete donaciones por cada mil habitantes año un trece coma cinco por debajo de la nuestra en este momento de acuerdo a la organización mundial de la salud la tasa media de donación en los países desarrollados está alrededor de treinta y ocho donaciones por cada mil habitantes año cifra también inferior a la nuestra la tasa de utilización

principal componente a la hora de determinar las necesidades de un país es extremadamente variable dentro de los países de nuestro entorno por ejemplo dinamarca transfunde el doble de este componente que holanda cuando ambos países disponen de servicios sanitarios de primer nivel

a la de noruega y con niveles de utilización inferiores a finlandia

y superiores a italia australia reino unido francia holanda o canadá

se están implantando numerosas iniciativas en todos los países para garantizar el uso óptimo de los hemoderivados lo que está provocando una disminución de la donación muy similar en todos los países del entorno europeo pero también hay que decir que gracias a las nuevas tecnologías médico quirúrgicas menos invasivas en muchas casos

el umbral clínico y analítico para determinar la necesidad de una transfusión está disminuyendo zentzu horretan gure erkidegoko

da a pesar de que tanto la disminución de la demanda como de la oferta

pacientes de nuestro entorno es claro que no debemos relajarnos ya que podría repuntar fundamentalmente debido al creciente envejecimiento de nuestra población que es el principal factor para el consumo

también un incremento de la cirugía ortopédica y ambos dos son

sus patologías en los últimos diez años las expectativas de vida de vascos y vascas han mejorado y así como la actividad transfusional

la población susceptible de ser transfundida aumenta cada año por los criterios de transfusión más o menos restrictivos que se utilizan ahora tienen un impacto en las necesidades de donación las solicitudes de transfusión de hematíes han disminuido en los últimos cinco años

los hospitales en los que es más evidente esta disminución son los de cruces y donostia pese a que se actividad es más compleja

edota bizkortze zerbitzuetan así por ponerle un ejemplo el servicio de urgencias del hospital

ha pasado de transfundir de tres a dos coma siete unidades de media por paciente en aquellos que

ha bajado de cinco a tres coma siete unidades de media por paciente también en aquellos a los que se les indica una transfusión por contra el colectivo donantes de sangre es estable y muy regular más del ochenta y cinco por ciento de las donaciones proceden de donantes habituales

pero hay una serie de factores como hemos dicho que pueden incidir negativamente en la actividad el envejecimiento de la población donante

y los nuevos nacimientos y también el actual reordenamiento social y laboral

valorar que una parte importante de las colectas de donación se realizan en los entornos laborales y estos entornos son cada vez de más difícil acceso para el centro vasco de transfusión

en todos los países desarrollados aunque se disponga de un sistema de donación

de forma periódica existen situaciones de crisis que provocan carencias más o menos agudas

los momentos más delicados son habitualmente los meses de enero y verano coincidiendo

especialmente en enero y problemas de vacaciones prolongadas también de vacaciones para los donantes especialmente en verano además

hasta hace unos años se limitaba unos días en navidad y en el mes de agosto pero actualmente los hábitos sociales y familiares son diferentes y estamos viendo que el impacto de la donación baja desde junio hasta bien entrado septiembre la donación en julio disminuye como media un quince por ciento

y un cuarenta por ciento egoera horri aurre egiteko

eman a pesar de los intentos del centro de ir minimizando estas tendencias se puede afirmar categóricamente que de momento no ha habido carencias

y que en ningún caso se han provocado modificaciones de la actividad asistencial ni especialmente de la actividad quirúrgica y no es una novedad de este año sino que viene siendo así ya en las dos últimas décadas y aunque se cierto como bien usted ha recordado que las últimas semanas

es debido a que de hacerse más adelante metidos más en julio y en agosto su eficacia había sido mucho menor pero nuestros almacenes en la actualidad

y tienen unos niveles normales para entender la función del verano lo cual no quiere decir

no venga también especialmente bien pretendemos comenzar el mes de julio con una situación adecuada para minimizar los efectos que el verano sin duda

las medidas que podemos tomar son limitadas también debido a la caducidad de los componentes hemáticos pero existe margen de maniobra lo que no quita que recordar la importancia de la donación y lo escaso e importante que son los hemoderivados y que son difícilmente

por otros productos nunca está de más por esto le vuelvo a reiterar el agradecimiento por la pregunta eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

presidenta y brevemente también en primer lugar para agradecer las explicaciones

alerta y tenemos que seguir trabajando en las claves desde luego en las que lo ha hecho el centro y las asociaciones de donantes que yo creo que eso

de nuestras asociaciones de donantes de sangre en euskadi por precisamente tener siempre y romper todas las barreras y superar todos los rankings efectivamente euskadi siempre ha estado por encima últimamente nos supera extremadura y castilla y león

el índice de recogida pero efectivamente ahí estamos porque como usted ha dicho por encima de la media

son campañas el llamamiento permanente pero tiene que haber algo

es necesario esa cultura esa cultura que hemos tenido y que los vascos conocemos bien de la donación y efectivamente en álava por ejemplo ha sido ha llegado a ser la mejor zona del mundo en recogida de sangre por habitante en ese sentido yo creo que

cuando hablaba yo con responsables de asociaciones sigue siendo también

público de salud sino en el ámbito educacional efectivamente

social en relación con la crisis económica y el hecho de

y el envejecimiento de la población también entonces la cultura del joven que quiera ser cuando sea mayor donante yo creo que eso también hay que instalarlo en la sociedad o sea que ahí están las claves

estamos descendiendo en donaciones no hay preocupación por nuestras reservas

pero sí que tiene que haber un impulso a la donación una cultura de la donación saber que son las necesidades no solamente la solidaridad

sanitarias y las necesidades médicas y las necesidades de la población que
pueden estar en riesgo en cualquier momento yo creo que es ese sentido tenemos que seguir trabajando por ahí muchas gracias eskerrik asko

muy importante hacer un recordatorio periódico cualquiera puede necesitar sangre en un momento concreto y la sangre solo viene de la donación que hacemos las personas y es un ejemplo de solidaridad en el que siempre hemos destacado coincido con usted

tres asociaciones territoriales de donantes de sangre periódicamente

y que es una cultura que hay que intentar no perder y sobre todo fomentar a nivel de juventud que es lo que va a permitir

donando y reiterar que el centro vasco de transfusión y tejidos humanos cuenta con reservas suficientes para afrontar los meses de verano y que a día de hoy no existe un riesgo

lo cual no quiere decir que cualquier donación sea bienvenida y que además no estamos exentos de en un momento determinado tener un accidente

quienes afirman que esta es la situación real y se muestran tranquilos de cara a los próximos meses zentroko arduradunek diotenez hori da benetako

asistencial pueda verse modificada por este motivo este verano y volver hacer hincapié en que a pesar de que es cierto que la media anual ha descendido es en el ámbito del transplante de la donación

es bueno medir periodos largos y probablemente un periodo anual no es suficiente para ver una tendencia pero los parámetros en los que nos movemos en euskadi son equivalentes a los de los países

volver a recordar que en euskadi a fecha de hoy tenemos una media de cuarenta y dos donaciones por cada mil habitantes año que de acuerdo a la tasa media de la donación en países desarrollados es algo superior en euskadi siempre nos hemos caracterizado por la solidaridad

que demuestran el compromiso de vascas y vascos con quien más lo necesita deialdi berri bat luzatu nahiko nieke herritarrei denon laguntza beharrezkoa da

que ya llevan años sin duda son una parte fundamental de las tasas de donación de sangre de la que gozamos en euskadi por ello animarles a ellos también a que sigan desempeñando una labor de concienciación y apoyo y agradecerles su contribución bestalde ez nuke nire interbentzio hau amaitu nahi

eskerrik asko y para finalizar lanzar un mensaje de tranquilidad nuestros almacenes de hemoderivados

dentro de la normalidad desde hace décadas no se han producido carencias alarmantes ni ha habido modificaciones

de ahí que aunque estemos tranquilos sin duda lo más importante

y seguir permanentemente fomentando la donación de sangre agradeciendo a las personas que donan para poder continuar estando preparados para atender a todas las personas

el presente mes de mayo su viceconsejero de transportes

sigue lastrando algunos proyectos la línea cinco de metro bilbao sin duda es uno de ellos que se lo digan sino a los vecinos de galdakao que el pasado jueves volvieron a salir a la calle bajo el lema prioridad para galdakao línea bost

están en su derecho desde luego de exigirles que cumplan lo que fue un compromiso electoral del partido nacionalista vasco hoy responsable del gobierno vasco que

y que el pnv presentó a los ciudadanos en dos mil doce concretamente se trata del compromiso siete

claro que eso era lo que decían en dos mil doce en dos mil catorce usted misma dejaba claro tanto en el debate como en el trámite presupuestario como a una pregunta que le hice en este pleno

antes de tres años según palabras textuales suyas no había ninguna inversión contemplada para dos mil quince ni siquiera para dos mil dieciséis ni para dos mil diecisiete probablemente usted clarísimo señora consejera no iban a cumplir su compromiso electoral yo diría que fue usted hasta categórica ahora bien convendría que una de dos o de cara a dos mil dieciséis se replantearan sus incumplimientos y decidieran invertir en la construcción de la línea cinco de metro o en su defecto dejaran de confundir a los vecinos de galdakano con la posibilidad de que se vayan a licitar los trabajos de construcción en dos mil dieciséis o bi mila hamazazpi

en esa misma entrevista a la que me he referido antes ante la pregunta de si en dos mil dieciséis podrían licitarse los trabajos dice que habrá que hablarlo con la diputación

pues dice lo mismo bueno que habrá que hablarlo con la diputación insiste

puede que no balones fuera descartamos definitivamente el impulso de la línea cinco para los próximos tres años ante todo ello

en vano le insisto y le pregunto si forma parte de los criterios prioritarios del gobierno vasco

sí en relación al proyecto de línea cinco del ferrocarril metropolitano de bilbao le puedo decir que estamos trabajando en el desarrollo del proyecto y en este sentido indicaré las tareas que estamos desarrollando el veinte de abril de dos mil quince se ha aprobado con carácter definitivo el estudio informativo

en estos momentos además estamos desarrollando la tramitación ambiental entre galdakao centro y hospital y además estamos llevando a cabo también un estudio

ello nos va a permitir seguir trabajando en la redacción de los proyectos constructivos y de instalaciones de ambos tramos que es otra de las tareas que también en estos momentos estamos realizando y además efectivamente como usted indicaba y como también reflejaba el viceconsejero señor aiz en alguna entrevista

infraestructura deberemos llevar a cabo la articulación de un acuerdo interinstitucional al igual que en otras líneas de ferrocarril metropolitano
para determinar la financiación de las obras y la posterior explotación de esta línea eskerrik asko

haciendo ya lo conocíamos y también que eso casualidad también más o menos ha coincidido con época preelectoral pues a lo mejor ha dicho a los vecinos del galdácano

en cuanto a que la construcción del metro iba a ser antes de lo previsto yo le pregunto

pero es que los vecinos no siguen manifestándose y siguen

a pesar de su anuncio de mayo lo han hecho la semana pasada entonces yo lo que

tan categórica que diga que no que es que a pesar a de esos estudios ambientales a pesar de los estudios

no va a haber inversiones para el metro para la línea cinco

ni en el dos mil dieciocho y por rigores presupuestarios

cuando le pregunta un día sí y otro también al gobierno de españa por otras inversiones en el país vasco

y luego también ahora un elemento nuevo la variable no hay que hablarlo con la diputación es que yo cada vez que recuerdo las broncas entre partido nacionalista vasco y partido socialista a cuenta

pues ahora que tan bien se llevan pues espero que puedan acelerar

hemos sufrido los efectos de la crisis y eso se ha notado en las inversiones eso es evidente y lo conoce usted

en los trabajos previos necesarios para desarrollar esa línea cinco del ferrocarril metropolitano de bilbao

los proyectos el estudio informativo los proyectos las evaluaciones ambientales etcétera son los que nos definirán el precio o el importe

y también la articulación del acuerdo institucional nos dirá hasta dónde tendremos que poner recursos de este gobierno de este departamento y de la diputación le recuerdo que en otros casos como por ejemplo el de la línea tres efectivamente hay una financiación compartida que ha permitido dar un impulso por esa financiación compartida entre la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco dar un impulso a esa línea

con los créditos necesarios y con el calendario perfectamente claro de cómo van las obras con la línea cinco estamos trabajando de esa misma manera buscando los compromisos los créditos los acuerdos para poder hacer ese calendario y esa planificación eskerrik asko

los constructores iniciaron solo setenta y nueve viviendas en dos mil catorce en álava

otras dos cuestiones fundamentales que quisiera dejar encima de la mesa la territorialización de la capacidad residencial se efectúa por medio del planeamiento municipal indicándose la prioridad de ubicarse

en suelo ya urbanizado o ya urbanizable en definitiva la idea fundamental que subyace

es terminar de colmatar el suelo urbano y siguiendo con el ejemplo de vitoria gasteiz que usted mismo ha puesto en esta tribuna la modificación supone una capacidad máxima de veintiséis mil ciento ochenta y tres viviendas en un municipio que ya tiene veintiocho mil ochocientos treinta y ocho pendientes de ejecutarse clasificadas

a la baja y lo que ajustada a las necesidades actuales hace que no sea necesario proponer nuevos desarrollos por tanto

que se plantea está perfectamente ajustada en la línea de la sostenibilidad y de no seguir artificializando territorio también tengo que decir que la actividad de ordenación del territorio de este gobierno y de este territorio ha hecho que la actividad edificatoria

haya tenido un impacto muchísimo más pequeño que en el resto del estado español y no tiene usted más que ir a las estadísticas y a los números para poder darse cuenta de ello insisto en cualquier caso estamos iniciando la revisión de las directrices